el programa marco fue aprobado por el gobierno en enero del pasado año forma parte de la planificación estratégica de desarrollo humano y crecimiento sostenible de esta legislatura el objetivo nuclear del gobierno es impulsar el empleo y la reactivación económica a través de la estrategia

innovación industrialización internacionalización e inversión pública hemos comprometido seis mil cuatrocientos setenta y cinco millónes de euros hasta el año dos mil dieciséis con el compromiso de incentivar la creación

esta semana hemos finalizado la evaluación del primer año constatamos que la inversión ha comenzado a dar frutos en términos de empleo y dinamización económica

seiscientos millónes de euros en avales se han destinado trescientos setenta y seis millónes a la innovación

en términos de empleo se ha incentivado la creación de once mil ochocientos empleos lo hemos logrado a través de cuatro ejes

incentivos a la contratación de personas con dificultades de inserción programas de rehabilitación en el sector de la construcción y programas de apoyo al autoempleo y la creación de pymes

han contribuido a paliar los efectos negativos de destrucción de empleo provocados por los coletazos de la crisis este programa continúa con nuevas medidas de apoyo a la empresa y a la ejecución de los planes de empleo así este año se ejecutarán

seiscientos millónes de avales vamos a destinar doscientos cincuenta y ocho millónes al plan de empleo y nuestra previsión es que se incentive la creación de once mil nuevos puestos de trabajo euskadi vive

crecer no significa salir de la crisis pero supone avanzar en la buena dirección y abrir oportunidades a la generación de empleo va a ser

de políticas sostenidas y de esfuerzo compartido con las empresas la creación de empleo volver a los parámetros anteriores a la crisis será fruto

mantengan la dinámica de crecimiento en los mercados internacionales e impulsemos nuevos sectores económicos hoy

la base para la creación de empleo sostenida la función del gobierno va a seguir siendo facilitar las condiciones ayudar a las empresas y ser ejemplar

lehendakari legebiltzarkideok egun on desde el gobierno en este tema la muerte de iñigo cabacas y el esclarecimiento de las circunstancias

siempre hemos marcado dos prioridades por un lado la judicial y política para el esclarecimiento de los hechos

iñigo y por tanto la absoluta colaboración con la investigación judicial pero al mismo tiempo el aspecto

especialmente con los padres mire desde mi incorporación al cargo en diciembre del dos mil doce

los padres como con el entorno de iñigo cabacas encuentros que se han producido siempre en el ámbito de las relaciones personales desde la discreción en la privacidad y siempre con el deseo y la voluntad de acercarme y solidarizarme con la realidad con su dolor

me hubiera gustado que esos encuentros hubieran seguido en ese ámbito en el ámbito de la discreción en el ámbito de las relaciones personales pero al mismo tiempo

entiendo y acepto que los padres de iñigo cabacas que manu y fina critiquen valoren esos encuentros incluso hagan manifestaciones están en su perfecto derecho

la desolación y lo comprendo porque comprendo su dolor por eso no puedo aceptar lo que usted está haciendo estos días señor arzuaga qué aporta al esclarecimiento

el dolor la utilización del dolor de los padres qué aporta utilizar el dolor como

y contra los miembros del gobierno descontextualizando palabras de situaciones que usted no conoce porque usted no estuvo allí

el apoyo personal son iniciativas que ni yo personalmente

siempre y cuando los padres de iñigo cabacas así lo acepten y así lo quieran eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea arzuaga jauna zurea da hitza

si no es por boca de manu y de fina y por eso le pregunto a usted

pero ellos han decidido hacerlo público seguramente porque no podían más

el departamento de seguridad y el propio jonan fernandez no actúan como observadores imparciales no son espectadores objetivos que ven un hecho y que opinan sobre él no son neutrales el gobierno vasco y el departamento de seguridad es el responsable último del delito que se perpetró contra iñigo cabacas es su responsabilidad

adopta un papel exculpatorio cuando no de minimizar precisamente

delito que se perpetró contra iñigo cabacas cuando solicita a la familia de iñigo cabacas que se resigne y pierda la esperanza de recibir justicia

actúa como encubridor de las responsabilidades del departamento de seguridad cuando le solicita que no se busquen enemigos suena además amenazante usted dice que actúa con discreción y con privacidad para paliar el sufrimiento de la familia de iñigo cabacas pero yo considero que muestran muy poca

humanidad porque no es además una mera cuestión de palabras es una cuestión también de hechos nos habla de que colabora con la justicia sin embargo hay datos que

como parte en la instrucción del caso y no está realizando ninguna actuación ninguna propuesta a favor de esclarecer no está realizando ningún esfuerzo para que la investigación siga adelante cuando no está entorpeciéndola nula empatía nula sensibilidad pero además nula actuación y nula efectividad me echa en cara usted

cabacas y yo le digo que no es así trabajo honestamente por procurarles verdad

entiendo que solo la verdad y la justicia paliará su sufrimiento y entiendo también que cada vez están más lejos de que esto llegue a un

para conseguir verdad y justicia reflexione por qué tienen esos sentimientos negativos hacía ustedes sentimientos negativos por sus palabras por sus hechos

si tiene pruebas y tiene argumentos para criticar

nadie le va a negar su derecho a la crítica o a la denuncia y menos aún cualquier aportación que pueda hacer para que se haga justicia y se haga ya nadie se lo va a negar pero ese no es el camino que emprendió el lunes con la rueda de prensa no es el camino

palabras y expresiones que no le pertenecen insisto está exigiendo explicaciones de conversaciones privadas en las que usted no estuvo me pide que yo explique

está utilizando palabras que nacen del dolor de unos padres

para qué para qué usted no tiene derecho a utilizar conversaciones privadas porque no estuvo presente

porque no participó son conversaciones que desconoce

mire hay dos maneras de acrecentar el dolor de las víctimas la primera es

pasar de largo e ignorarlas la segunda es hurgar en su dolor

con fines partidistas y oportunidad electoral ambas formas son absolutamente detestables eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros parlamentarios buenos días a todos quiero comenzar felicitando al señor consejero por su nueva condición de líder sindical

pero claro le falta medir que la huelga es un derecho que reside en los ciudadanos no en sus gobernantes y también le falta reconocer por qué hemos llegado aquí

que afecta a los servicios que deben recibir los ciudadanos que es de lo que debe hablar un consejero no sobre el momento en el que se puede o debe convocar una huelga

explicar a los ciudadanos cómo va a hacer posible ahora y en el futuro que la sanidad siga siendo universal gratuita y de calidad claro

en el acuerdo y digo bien orientado porque como ya se ha explicado en más de una ocasión lo que aquí hacemos son orientaciones

porque ya el pasado treinta de octubre acordamos mayoría parlamentaria que queríamos seguir garantizando la asistencia sanitaria universal gratuita y de calidad para todos los ciudadanos vascos y acordamos que para conseguirlo el gobierno debía negociar y acordar en mesa sectorial

por lo tanto debía incrementar las tasas de reposición de las bajas por jubilación por incapacidades permanentes o por fallecimientos

el relevo generacional recuperar el espíritu de acuerdo del año dos mil de las treinta y cinco horas y otras medidas de fomento del empleo

transformar en estructurales todas las plazas que lleven como eventuales tres años o más en esa situación repito que decidimos que el gobierno debía negociar y acordar que no son palabras sinónimas sino complementarias el acuerdo es resultado de la negociación a la vista está

y por eso le preguntamos qué decisiones piensa adoptar para cumplir los acuerdos parlamentarios

egun on guztioi señora roncal me pregunta usted qué decisiones vamos a adoptar para cumplir acuerdos parlamentarios en aras a mejorar los servicios sanitarios y tengo que comenzar diciéndole

está fuera de toda duda si usted es usuaria del servicio lo sabe osakidetzak dagoeneko pertsona guztientzako

para cumplir los acuerdos parlamentarios a los que usted ha hecho alusión en referencia a la enmienda transaccional de dos mil catorce no se están pensando

semanales que tienen derecho a la reposición que va a hacer usted una ope

por jubilaciones o por invalideces o por fallecimientos debería usted haber anunciado eso en prensa y a los propios convocantes y debería haberlo trasladado a mesas sectorial estoy segura que hubiera habido un acuerdo y desde luego debería habernos informado a los parlamentarios que ya había cumplido con eso

pero lejos de eso usted está teniendo un discurso absolutamente temerario con respeto a los trabajadores públicos está hablando de privilegios

para cubrir esos servicios públicos con la calidad y la exigencia ciudadana ni de las condiciones de los que ofrecen y prestan esos servicios no le oigo hablar de cómo trabajan quienes educan a nuestros hijos quienes vigilan nuestra salud quienes velan por nuestra seguridad

en cambio le oigo hablar en general a ellos de la falta de voluntad de acuerdo de ustedes de usted y del resto de su gobierno porque ustedes sí que dicen discursos de voluntad de acuerdo y luego ni descuelgan el teléfono para ponerse en contacto con nadie y eso lo vimos exactamente ayer

sobre los puntos concretos de la enmienda transaccional el primero respeto a la suficiencia de recursos humanos cuando se aprobó el texto

una ope para dos mil catorce otra para dos mil quince una ampliación de plantilla

apuestan por la creación de empleo estable y de calidad la prueba es que

hemos llegado y no sin dificultad al techo que establece la normativa básica algo de lo que usted es perfectamente consciente como lo es de la inseguridad jurídica

que rebasara el máximo legal permitido como usted sabe en relación a este tema le recuerdo que respeto a la tasa de reposición en el año dos mil nueve siendo presidente del gobierno de españa el señor rodríguez zapatero la ley de presupuestos del estado estableció que el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público sería

el partido socialista señora roncal al año siguiente dos mil diez

rebajó la tasa de reposición hasta el quince por ciento el partido socialista señora roncal

hasta el diez por ciento en cuanto a la elaboración de un plan de empleo

cuenta desde el dos mil catorce con un plan de ordenación de recursos humanos pactado y suscrito con el sindicato médico de euskadi

debe ser general y para el conjunto de la administración en cuanto a la congelación salarial

básica y que ustedes la aplicaron a partir de dos mil once después de bajar los salarios un cinco por ciento en el dos mil diez se saltaron ustedes la normativa del estado pagando la extra de diciembre del dos mil doce tampoco cobertura de sustituciones en febrero la dirección de osakidatza presentó una oferta en la mesa sectorial

pero no hay ninguna administración ni en euskadi ni que yo conozca fuera de ella que sustituya el cien por cien desde el primer día

cuando ha sido gobernada por nosotros y por ustedes tampoco lo ha hecho seigarren eta azken puntua osakidetzak egina du azterlan bat

para mí la huelga de ayer lo considero un fracaso de nuestro sistema ojalá nos pongamos de acuerdo pero tenga usted un poco de memoria no han empezado ayer no le voy a volver a leer los días de huelga en su periodo señora roncal

para sacar réditos electorales eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

lehendakari señores y señoras consejeros consejeras señorías malas noticias ayer y hoy

independientemente de la incidencia los sindicatos se preocupan

los mejores de españa según ustedes señor consejero el departamento se preocupa por sus presupuestos y por sus necesidades y nosotros nos preocupamos

que tienen entre sindicatos y gobierno montada hace un buen tiempo pero los pacientes sufren colas retrasos aplazamientos suspensiones faltas de avisos etcétera etcétera etcétera por estas dos jornadas de huelga

en estas dos jornadas de huelga provocadas por esas discrepancias y diferencias existentes en esta legislatura

la última oferta de la dirección nuevo fracaso es decir los paganos

le preguntamos usted ha dicho que la huelga es irresponsabl e le preguntamos como valora la situación creada en el servicio

abducidos por los sindicatos en la presente convocatoria de huelga muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on berriro señor barrio la verdad es que esperaba otro tipo

postureo desde el departamento de salud del gobierno vasco desde la dirección general y desde la dirección de recursos humanos

hemos dicho en muchas ocasiones que no vemos justificada la conflictividad laboral que los sindicatos

propiciando en euskadi especialmente en el sector público y que usted por el partido al que pertenece debería conocer que la situación en este ámbito no es muy distinta

que entendemos no se da en este momento los sindicatos intentan confundir las condiciones laborales propias

pero los indicadores de salud de resultados de satisfacción de accesibilidad de trato

no hablan de un descenso en la calidad de la asistencia sanitaria que se presta somos conscientes que se ha aumentado la jornada laboral a mil seiscientos catorce horas si por ustedes fueran

están congelados y también aquí las políticas del gobierno de mariano rajoy persiguen que esto sea así pero las condiciones laborales y salariales de osakidetza no son malas

no dependientes de la administración pública aún así trabajamos para intentar ponernos de acuerdo

y pensamos que el modelo sindical tiene graves problemas de disociación con sus trabajadores eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna barrio jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta postureo señor consejero preocuparse por los pacientes y por los usuarios de

que precisamente se preocupa por eso parece que a veces por su tono no nos extraña que haga huelgas por el tono

señor consejero bueno pero tras el último fracaso de la última mesa de negociación y de las jornadas de huelga

como encaran ante el riesgo de más huelgas de más movilizaciones

de nuevo a los usuarios como afectados recordemos las anteriores movilizaciones huelgas las actuales

qué actitud tienen ustedes y los sindicatos en relación con todo esto

se ha modificado en algo la suya la de los sindicatos no sé cuéntenos yo veo que sindicato médico

comisiones pues parece que tiene un discurso más razonable más profesional incluso otra disposición

a saco a saco señor consejero no son capaces ustedes ya que comparten ideología nacionalista afinidades

de radicalidad en el discurso de ela y lab no son ustedes capaces de hacerlo vamos hay una disociación yo creo la incidencia de la huelga lo dice una disociación también a veces entre los sindicatos

eso tenemos que valorar de todas maneras yo le decía lo de ela y lab y ese discurso nacionalista radical pero es que hay que comparar los representantes de ela hablando

como un chantaje puro y duro nos obliga a gritar decía el representante de ela

hablan más de voluntades de acuerdos hablan más de intención de mejorar y de negociar es decir

alguien le habla desde el corazón que no enfadado el gobierno vasco el departamento de salud y osakidetza ni deben

en que estamos inmersos el conjunto de la sociedad la situación económica de euskadi está mejorando es un hecho aunque queda camino por recorrer podemos hablar de recuperación de signos de recuperación

y los del resto del sector público vasco de euskadi al menos esta es la voluntad del gobierno

gracias a su trabajo y a su compromiso somos capaces de ofrecer un servicio público y de calidad respaldado y altamente valorado por la sociedad vasca aún así no estamos satisfechos de la situación actual creemos que es necesario llegar a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de osakidetza

propuestas relevantes señor barrio oferta pública de empleo reactivación del desarrollo profesional acuerdo para cobertura de sustituciones

mejoras en los sistemas de transparencia y control en la contratación temporal etcétera pero es cierto

parece ser que nada es suficiente y cualquier propuesta que no pase por recuperar las condiciones laborales de dos mil diez aumentando sueldos y reduciendo

a pesar de que suponga una mejora real y efectiva sobre las condiciones laborales de miles de trabajadores

si uno no quiere no tenga usted ninguna duda de que nuestra voluntad es de entendimiento y estaremos hasta el último minuto de esta legislatura

sí gracias presidenta un poco de agua por favor para el señor darpón

después del esfuerzo realizado señor lehendakari covite ha presentado una denuncia contra cinco militantes de la banda terrorista eta

por la realización de estudios en la upv la denuncia se motiva en que al parecer habrían obtenido de forma irregular por lo que se denuncia una supuesta falsedad documental en concreto uno de ellos realizó el examen de acceso a la universidad diez años después

a los estudios superiores otro estudió una carrera sin haber superado el examen de acceso para mayores de veinticinco años

y una fecha de examen de acceso para mayores de veinticinco años falseada en la demanda de covite se pide que se impongan las condenas que correspondan por el delito de falsedad documental

o los estudios universitarios cursados de modo fraudulento la demanda pide también que se revisen todas las ejecuciones de sentencia

de estudios más allá de lo que determine la fiscalía entorno a la denuncia del colectivo de víctimas interesa conocer

sobre este anómalo funcionamiento de la upv ya que si los mecanismos de control de la misma hubieran funcionado correctamente no se hubieran producido esas irregularidades y esas irregularidades se han producido hay datos que así lo demuestran y las consecuencias las estamos sufriendo ahora en los últimos tiempos en las últimas semanas en los últimos meses

presos de eta como consecuencia de haber obtenido beneficios penitenciarios por estos hechos por lo tanto interesa conocer la opinión del gobierno en relación a esta cuestión y en fin qué es lo que estaría dispuesto a apoyar el gobierno para aclarar todo ello me parece que es un tema

ahora por lo tanto es un tema actual en fin le pregunto también directamente al gobierno si apoyaría que estos hechos pudieran ser investigados

hoy al gobierno tiene una única justificación la de meter ruido e infundir sospechas en un periodo preelectoral en el que nos encontramos en todo caso le responderé con tres simples afirmaciones objetivas en primer lugar ni la universidad del país vasco

que en ningún caso es competente en esta materia ha recibido notificación oficial alguna en relación al tema que usted nos plantea en segundo lugar la única información de que disponemos al respecto aparte de la difundida por los medios de comunicación es la publicada por covite en su página web según dicha información el colectivo de víctimas del terrorismo ha presentado una denuncia penal contra cinco etarras que no contra la universidad del país vasco ni contra este gobierno

por tanto señor maneiro habrá que ver cuál es el posicionamiento del tribunal mientras tanto este gobierno no tiene nada más que decir al respecto eskerrik asko

sino denunciar unos hechos que efectivamente han ocurrido investigar saber qué es lo que ha ocurrido en la upv durante décadas cuyas consecuencias las estamos pagando ahora

que como consecuencia de la obtención fraudulenta de beneficios penitenciarios

es un asunto de extraordinaria importancia usted dice que los hechos no los conoce se los cuento yo la denuncia es contra cinco militantes de eta cinco

decenas y los va a conocer en breve espacio de tiempo decenas de presos de eta que accedieron a beneficios penitenciarios de manera fraudulenta

de una estrategia diseñada por no se sabe exactamente quién aunque lo suponemos para que desde dentro de la upv se pudieran conceder títulos universitarios el asunto efectivamente es de gran alcance y va a tener recorrido

en este parlamento por lo tanto yo mismo me voy a poner en contacto

de este parlamento para tratar de poner en marcha una comisión de investigación para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido en la upv

señor maneiro como le he dicho al final de mi primera intervención habrá que esperar a ver qué es lo que dice el tribunal

realiza un importante esfuerzo para garantizar la calidad y seguridad de los estudios universitarios de todo el alumnado en el tema concreto que hoy nos trae usted

están hoy en día garantizadas mediante un protocolo aprobado por el consejo de gobierno de la universidad del país vasco el veintiocho de octubre de dos mil cuatro por unanimidad ratificado por la sentencia doscientos seis barra dos mil once del tribunal constitucional y actualizado por el consejo de gobierno de la universidad del país vasco el dieciocho de julio de dos mil trece también por unanimidad

por lo tanto señor maneiro le rogaría un mayor rigor en sus argumentaciones con el fin de no confundir a la ciudadanía ni perjudicar la imagen de la universidad del país vasco que está llevando a cabo una magnífica labor en este ámbito sea más riguroso en sus declaraciones que no parecen tener más
que tener un claro fin electoralista eskerrik asko uriarte

mariano rajoy ha sido desaprovechada para la concertación del modelo de estado a pesar de que el partido popular decía usted ha tenido todas las bazas para un entendimiento sobre el modelo de estado que incluya la singularidad de cataluña

literal y yo le vuelvo a preguntar lo que ya le he preguntado en varias ocasiones en este parlamento cuál es el modelo de estado que defiende cuál es el modelo de estado que defiende el partido nacionalista vasco cuál es el modelo de estado que defiende el gobierno vasco

si es que se sentirían cómodos en algún modelo de estado qué reformas concretas propondrían ustedes qué tipo de modelo de estado están ustedes

defenderían un estado federal asimétrico una confederación de esas que no existen en ningún lugar del mundo qué reformas legales propondrían cuáles serían los pasos cuál es el escenario final en el que ustedes se sentirían cómodos si es que ustedes se sentirían cómodos en algún escenario

con qué otros grupos creen ustedes factibles pactar para defender aquí o allá ese modelo de estado aquí en euskadi o en el conjunto de españa

qué implicaciones tendría para la sociedad vasca cuándo van a plantearlo apunta a un modelo de estado que incluya la singularidad de euskadi no es a día de hoy euskadi tratada de manera singular respecto

en qué habría que cambiar esa singularidad hacia dónde habría que ir a qué más aspiran cuándo van a plantearlo cuándo van a iniciar

con qué apoyos cuentan necesitamos que ustedes nos respondan a todas estas preguntas y además necesitamos conocer qué es exactamente lo que usted defiende y lo que defiende el partido nacionalista vasco necesitamos y vamos a volver a plantearlo

claramente porque efectivamente nosotros también nos parece un debate muy interesante el debate sobre el modelo de estado y la posible reforma de la constitución española a nosotros nos parece un debate muy interesante pero nos parece también muy interesante y muy necesario

de manera clara en lugar de jugar a varias bandas como habitualmente e históricamente ha hecho el partido nacionalista vasco es decir

a la ciudadanía algo que en demasiadas ocasiones e históricamente ha hecho el partido nacionalista vasco que hable con claridad exactamente qué es lo que quiere para cuándo lo quiere

objetivo durante estos dos años de estéril legislatura ayer tuvimos un nuevo ejemplo de la incompetencia absoluta de este gobierno usted en fin y ustedes han venido lanzando ideas aunque sin concretar nada y a veces planteando cosas distintas

pretenden usted y el gobierno vasco qué pasos piensan dar cuándo cómo y con quién y si piensan respetar o vulnerar la legalidad vigente la cual es

y su modelo de estado debemos decidirlo el conjunto de los ciudadanos españoles usted y ustedes en los últimos tiempos han reclamado el derecho a la autodeterminación usted

el año dos mil quince usted y ustedes han hablado

han hablado también de nacionalidad vasca han hablado de nuevo estatus han hablado a su vez de cumplir íntegramente el estatuto han reclamado el derecho a decidir

alcanzar la independencia aunque sin poner fecha han hablado también de república vasca

con la corona de bilateralidad política de derechos históricos han hablado de la necesidad de reformar la constitución española

la constitución española han hablado de alcanzar un verdadero estado plurinacional han dicho en algún momento determinado que lo más importante ahora es superar la crisis

que el nuevo estatus nos ayudaría a salir de la crisis ya digo cosas prácticamente en algún caso divergentes han hablado también de que antes de alcanzar el nuevo estatus hay que cerrar

de eta han hablado de un pacto nacional entre vascos es decir durante todo este tiempo

no gobernar y además de no ocuparse de los problemas esenciales de la ciudadanía además de hacer una gala de una incapacidad absoluta para aprobar leyes

en algún caso divergentes poco claras han venido jugando a dos bandas y nosotros sí queremos saber exactamente a día de hoy cuál es el modelo de estado

tenemos claro cuál es el modelo de estado que nosotros defendemos upyd tiene claro el modelo de estado que defiende también parece claro que estos señores de mi izquierda quieren la independencia mañana

hoy por la tarde el partido socialista ha planteado un estado federal asimétrico y el partido popular se rumorea que anda tratando de pactar con ciu o alguna fuerza

configuración de un estado que pudiera conceder algún tipo de privilegio para cataluña en fin

qué es lo que piensa el partido nacionalista vasco y en concreto usted y el gobierno vasco sobre cuál es el modelo de estado que a día de hoy defiende

para alcanzarlo y en definitiva en qué modelo de estado usted o ustedes se sentirían cómodos creo que hay que dejar de engañar

creo que hay que hablar claro me da la sensación que algunos efectivamente son independentistas y otros son nacionalistas y sobre todo son nacionalistas que viven del cuento de seguir siendo nacionalistas pero que no terminan de concretar sus propuestas en fin

al menos a día de hoy qué es exactamente lo que piensa usted en relación a esta cuestión eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

efectivamente vuelve a preguntar porque esta es exactamente la misma interpelación que me planteó usted el día trece de junio de dos mil catorce y he respondido además en cuatro ocasiones a esta misma cuestión

en contestación a sus preguntas he tratado de explicarle reiteradamente los conceptos sobre los que se asienta nuestro modelo nuestro modelo el del partido nacionalista vasco he expuesto el procedimiento de trabajo

el nuevo concepto de acuerdo pacto y el respeto a los principios democráticos y estoy seguro de que usted recuerda que he hablado del procedimiento de trabajo

de todas las cuestiones que usted dice que nosotros hemos dicho en su contexto señor maneiro y porque creo o me ha parecido que se ha quedado usted corto le digo más de lo que usted ha dicho que hemos dicho he hablado del contexto de la nueva europa

de la interdependencia de la soberanía compartida he hablado de la aspiración de contar con voz propia en europa he hablado del concepto como le he dicho acuerdo pacto también de las aspiraciones legítimas

contar con mayor autogobierno y más soberanía he hablado de la necesidad de contar con un sistema de garantías de bilateralidad y del respeto al hecho diferencial vasco he hablado también de los principios democráticos del respeto a las decisiones adoptadas por el parlamento

y pactada mi preocupación señor maneiro es euskadi el modelo institucional y político asentado en los derechos históricos vascos entendidos como la constitución de los estados vascos desde un respeto a la pluralidad y con una concepción confederal

que usted dice que no existe en ninguna parte del mundo lo tenemos aquí

este modelo interno es el que podría proponer para el estado partiendo del reconocimiento y respeto a la plurinacionalidad que lo conforma quiero que entienda que

la clave es la relación que debe tener euskadi con el modelo que españa decida como más adecuado hoy se está asumiendo la necesidad

usted lo ha dicho ante la evidencia de que la fórmula del café para todos incluso ha resultado fallida

un modelo que asuma la realidad incontestable de que en el estado conviven diferentes naciones si no fuera así lo de las diferentes naciones a qué responde el término recogido en la propia constitución los términos que estamos planteando con realismo señor maneiro y conscientes del contexto que vivimos

del contexto en el que vivimos se asientan en garantizar una relación bilateral efectiva que reconozca a euskadi con los mayores niveles de autogobierno con voz propia en europa

con garantías de cumplimiento hacía mención en su interpelación al resultado para euskadi de la relación con el actual gobierno de españa y quiero comenzar diciendo que creo en mi labor como lehendakari basada en el respeto y en la colaboración institucional creo en el pacto y creo en el acuerdo político

es evidente que por la falta de compromiso del gobierno de españa esta ha sido una legislatura perdida para el autogobierno vasco no solo para su actualización y avance

que es una ley orgánica señor maneiro el modelo que quiero comienza por un estado

y respetar el autogobierno vasco cuando además ha sido expresamente ratificado por la voluntad mayoritaria del pueblo vasco el gobierno español hoy no cumple quedan por transferir a euskadi importantes competencias estatutarias este mismo parlamento así lo ha constatado y afirmado quedan pendientes transferencias fundamentales para planificar el futuro y mejorar el bienestar la gestión del régimen económico de la seguridad social

los servicios e infraestructuras ferroviarias los puertos o los centros penitenciarios por decir unos casos no es que aspiremos a gestionar estas materias señor maneiro no es que ya deberíamos de estar gestionándolas por ley

me pregunta usted por el modelo de estado por la posición del gobierno respecto al modelo de estado pues bien queremos un estado que cumpla queremos un modelo que garantice la capacidad de euskadi

a los tribunales para evitar leyes que invaden nuestra competencia de autogobierno esta legislatura hemos tenido que acudir a los tribunales para defender la capacidad de euskadi

trece recursos de inconstitucionalidad interpuestos cuatro conflictos positivos de competencias interpuestos cuatro conflictos en la jurisdicción contencioso administrativa

queremos un modelo de estado que garantice el cumplimiento de los pactos políticos y que cumpla

kontuan dituen akordioa idatzita dago maneiro jauna queremos por lo tanto un acuerdo

partiendo de un acuerdo interno proponemos un nuevo pacto con el estado y queremos que se cumpla así está escrito somos conscientes de que la sociedad vasca nos exige un especial ejercicio de responsabilidad

porque llevamos demasiado tiempo inmersos en un profundo contencioso un contencioso político que ha ido alimentando en una parte mayoritaria

una profunda insatisfacción colectiva a la que hemos de dar una salida la sociedad nos pide una solución para la euskadi de hoy para la nación vasca

un acuerdo abierto que incluya las fórmulas de respeto a la voluntad de la sociedad vasca expresada por los mecanismos de las democracias avanzadas

comprenda las realidades supranacionales que nos circundan y con las que debemos interrelacionarnos para construir solidariamente un futuro mejor

sí muchas gracias lehendakari efectivamente la última vez que le interpelé sobre este asunto fue hace un año una interpelación consecuencia

nosotros registramos una moción para que en esta cámara cada grupo político se posicionara en relación al modelo de estado que defiende porque nos parece efectivamente un tema

se posicione claramente y diga exactamente qué es lo que quiere y cómo va a pretender alcanzar esos objetivos

legítimos siempre y cuando lógicamente se respete la legalidad vigente por eso en fin no habría ningún problema pero cuando usted habla de respeto yo le tengo que recordar que

plantear en relación al modelo de estado o internamente en euskadi tiene que hacerse a través de los procedimientos legales establecidos y es lo que yo también le quiero recordar

y tiene que recordar por lo tanto que entre otras cuestiones el derecho a decidir en relación al modelo de estado corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles no sé si usted esto lo acepta o si piensa saltárselo

un año debatimos aquella moción de upyd en relación al modelo de estado y yo recuerdo que el partido nacionalista vasco no registró ninguna enmienda de totalidad a aquella moción al parecer porque se le pasó el plazo creo que es la primera ocasión en seis año y medio que llevo en este parlamento en el que al partido nacionalista vasco

iniciativa o una enmienda de totalidad en relación a una propuesta parlamentaria yo espero que cuando nosotros registremos esta moción el partido nacionalista vasco presente

en esta cámara qué es exactamente lo que defiende y cómo pretende alcanzarlo lo importante para mí en cualquier caso señor lehendakari

y todos los representantes institucionales hablemos con claridad y expliquemos a la ciudadanía qué es exactamente lo que queremos y ustedes han venido diciendo cosas

para después de salir de la crisis tratar de plantear un nuevo pacto entre vascos y después también dijeron que un nuevo pacto entre vascos o un nuevo estatus

y a continuación defendieron la posibilidad de pactar con la corona un nuevo estado en fin ya digo que son contradicciones permanentemente en este gobierno en usted y en el partido nacionalista vasco y yo creo que lo que tienen que hacer los partidos políticos es posicionarse claramente en relación a qué es exactamente lo que quieren que digan la verdad

frases retóricas o ideas generales sobre el escenario que se pretende alcanzar con el paso del tiempo sino exactamente qué es lo que se quiere y para cuándo y muy importante con quién con quién va a estar usted acompañado con qué apoyos cuenta para

ese nuevo modelo de estado o ese pacto político nuevo entre vascos a quién mira usted para alcanzar ese nuevo pacto qué características tendría ese nuevo pacto en qué beneficiaría a la sociedad ese nuevo pacto estos es lo que yo creo

que explicar ya digo el modelo de estado es un debate ciertamente interesante y nosotros vamos a volver a traerlo a esta cámara me parece que ese replanteamiento de modelo de estado produciendo y está en las agendas de los distintos partidos políticos pero evidentemente hay opiniones distintas señor lehendakari es decir no parece que todos los partidos políticos piensen como el partido nacionalista vasco hay algunos que piensan muy distinto y por lo tanto usted tendrá que reconocer

en minoría y por lo tanto tendrá que aceptar lo que se decida en relación a esa reforma de la constitución española y en todo caso yo lo que le quiero decir señor lehendakari

tiene que cumplir la legalidad vigente tiene que cumplir los procedimientos legales establecidos para modificar la legalidad vigente perfectamente claro debería quedar

condición que debe cumplir cualquier demócrata cualquier cambio que quiera plantearse a través de los

establecidos y sobre todo señor lehendakari decir la verdad

no decir una cosa en un determinado momento decir la contraria en otro determinado momento decir una cosa en el aberri eguna o decir una cosa distinta

señor maneiro en una pregunta anterior también

volver a insistir en algo que yo creo que es obvio en las respuestas a determinadas preguntas cuando las referencias que se hacen en las preguntas son descontextualizadas

en las propias preguntas incluso usted ha planteado el posicionamiento en relación al modelo de estado ha planteado el posicionamiento del partido nacionalista vasco

en su integridad incluso en las disposiciones para su posibilidad de profundización y avance

por qué en lugar de registrar mociones y de venir a plenos de control al gobierno vasco usted no se somete al ejercicio de la ponencia de autogobierno

en la ponencia de autogobierno en lugar de venir aquí a los plenos de control a anunciar que va a presentar mociones para que nos retratemos cuando ya estamos retratados con todo lo que tenemos escrito y ustedes también están retratados señor maneiro mire tengo muy claro que rechazo un modelo de estado

y me pregunta a quién mira usted pues se me hace difícil mirarle a usted y a upyd se me hace difícil políticamente

yo no puedo aceptar modelos empeñados en suprimir e incluso recortar poco a poco la capacidad política y de autogobierno de euskadi no puedo aceptar modelos que propongan acabar con el concierto económico

esencial para garantizar los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía yo me debo a euskadi y siempre defenderé los intereses de euskadi por eso defiendo el concierto económico

a lo que es un concierto político el reto colectivo de esta sociedad es alcanzar un nuevo marco de relación con el estado desde el reconocimiento y el respeto al hecho diferencial vasco usted ha constatado este hecho diferencial

lo que no se puede hacer es negar esta realidad quién está en minoría señor maneiro la cuestión vasca existe

no busque contradicciones una cosa son mis deseos y aspiraciones otra

y lo subrayo una mejora del autogobierno vasco como respuesta a una demanda mayoritaria de la sociedad una cosa son mis deseos y aspiraciones

y esta es la esencia de nuestra propuesta o de la propuesta acuerdo pacto soy perfectamente consciente de mi responsabilidad institucional como lehendakari tenemos una oportunidad que no hemos tenido con anterioridad para articular

nuestro planteamiento señor maneiro es transparente está escrito y se lo repito nuestro objetivo es alcanzar un acuerdo de normalización política

un modelo de convivencia así como un marco de relaciones con el estado en el que con mayor autogobierno es decir más soberanía

y las condiciones de lealtad este acuerdo de convivencia es necesario en euskadi y personalmente creo que además es posible

todo menos negar la evidencia de la realidad y renunciar a esta oportunidad

yo le tengo que agradecer de corazón la consideración hacia mi persona que supone el erigirme poco menos que en una especie de

en todas las administraciones públicas porque usted me pregunta en relación a una persona que desempeña funciones de responsabilidad pública en una sociedad

sujeta al código ético aprobado formalmente por este gobierno un ejercicio insisto puramente teórico porque no está sujeta

podría continuar perfectamente ejerciendo sus funciones porque es una persona que hasta donde yo sé

ni ha sido procesada ni ha sido demandada ni ha sido denunciada y en el procedimiento al que usted se refiere además no ha sido ni tan siquiera citada para declarar como testigo porque era un procedimiento que no era ni penal era un procedimiento laboral que se tramitó ante la jurisdicción social

y su opinión me parece muy válida más que nada porque usted también opina de cosas

según usted haber opinado anteriormente pero me gustaría abrir un poco el foco porque si abrimos el foco

cuando ha desempeñado su responsabilidad en este caso en e i te be podemos ver varias cosas varias cosas importantes yo creo a la hora de poder decir si una persona que está

por lo menos señalada con el dedo y que ha sido también acusada por haber hecho

cuando era gerente de e i te be a través de la empresa eme cuatro efe yo creo que es importante y es importante saber y sobre todo con esta ampliación del foco ver qué ha sucedido y qué ha sucedido en e i te be habría que recordar y para ser sinceros que se le intentó

una causa que ha sido sobreseída por la cual se le intentaba acusar de malversación de caudales públicos y delitos societarios y más allá de que no se le pueda

usted convendrá conmigo que el gasto que supuso su mala gestión para e i te be fue considerable y que eso sí atañe a este gobierno

por la gestión de esta persona por la mala gestión de esta persona posteriormente

y de vilau media habría que recordar los problemas laborales de estas dos empresas

y está en ere pero es que las conexiones entre estas dos empresas son bastante interesantes porque mientras que los y las trabajadoras de eme cuatro efe soportaban un ere sobre sus espaldas

a eme cuatro efe es decir cuando se quería recortar el coste salarial de los y las trabajadoras los directivos

empresa creada al amparo de e i te be ambas dos pasaban a formar parte

casualidades de la vida también habría que recordar es una empresa que está imputada en el caso de hiriko y por algo que es bastante interesante por haber cobrado sin realizar su trabajo o trabajo alguno con lo cual si tenemos en cuenta

que está imputada por haber cobrado dinero público sin haber realizado trabajo alguno y que la persona

era uno de los responsables la pregunta creo que tiene toda la intención y es absolutamente válida una persona así usted cree dentro de su código ético

que puede estar como director o gerente de cualquier entidad pública nosotros tenemos claro que no aunque no sea ni porque se le haya imputado o no

euros que ha sido señalada con el dedo por haber hecho cesión ilegal de trabajadores puede estar

una entidad pública si usted cree que sí el problema con el código ético seguramente no lo tendremos el resto el problema con el código ético lo tienen ustedes que a los suyos el código ético no le aplican porque lo único que es ético para usted

mucha diferencia de criterio no debemos tener si usted es coherente con la formación política a la que pertenece porque mire hace dos meses

sostuvo exactamente el mismo criterio dijo que hasta que se produjera cuando menos una imputación no era pertinente tomar ninguna medida en relación con un cargo público exactamente el mismo criterio ella era más allá luego no se acordó esto se acordó en juntas generales que hasta la apertura del juicio oral no procedía tomar ninguna medida por lo tanto el criterio debe ser

de la afiliación de las personas también hay otra consideración que es preciso

hay un cierto halo de sospecha que pretende proyectar usted sobre la gestión laboral

que contrasta abiertamente con esa pretensión y es que la gestión laboral de e i te be durante aquel periodo se consensuó amplísimamente contra la representación sindical creo que a usted le consta esto durante los años comprendidos

se firmaron veintisiete convenios colectivos para las tres sociedades del ente que suscribieron todas las

y los acuerdos suscritos contaron con el aval del consejo de administración de manera unánime con la participación y el voto favorable

coalición en este momento por tanto ni los criterios son tan diferentes objetivamente analizados más allá de las afiliaciones de unos y otros

consensuada hasta su último extremo con la representación sindical y con el consejo de administración yo

me está hablando de una persona que desarrolla su gestión en otra institución y

de proyección universal para hacer planteamientos éticos en relación con todos los cargos del mundo eskerrik asko

pero la pregunta es evidente la semana pasada este parlamento aprobó una iniciativa

en relación a la causa judicial abierta contra los promotores de este proyecto

en concreto este parlamento instó al gobierno vasco a personarse como perjudicado en la querella formulada por la fiscalía provincial de álava ante el juzgado de instrucción número tres de vitoria contra promotores del fracasado proyecto hiriko queremos preguntar por lo tanto al conjunto del gobierno si el gobierno vasco va a cumplir este mandato parlamentario

en la causa abierta en los juzgados de vitoria ya digo el mandato parlamentario ha sido prácticamente unánime salvo el partido nacionalista vasco

esta iniciativa de upyd es evidente cuál tiene que ser la respuesta del gobierno en mi opinión tiene que anunciar que finalmente ha decidido personarse como perjudicado

señor maneiro no sé ni para qué me pregunta si usted mismo se ha respondido en cualquier caso

que tiene como uno de sus principios fundamentales desde luego el máximo respeto a este parlamento no cabe otra respuesta a su pregunta que decir que vamos a cumplir el mandato parlamentario beraz

egun on guztioi consejera no debería de ser necesario que yo presentara hoy esta interpelación

de la industria vasca un elemento imprescindible para la competitividad para la internacionalización el disponer de productos tecnológicos de alto valor añadido es imprescindible en fin qué le voy a decir

pero resulta que los hechos contradicen sus palabras y por eso estoy aquí

piden que este gobierno se comprometa de manera suficiente

porque la situación es difícil y el gobierno habla asiduamente pero no garantiza el futuro

durante toda esta legislatura y eso es un hecho el caso es que en los últimos veinte años euskadi siempre ha subido

esa tendencia el gobierno anterior en los peores años de la crisis y con un presupuesto muy a la baja alcanzó el dos coma seis por ciento en dos mil doce situando a euskadi por primera vez por encima de la media europea

por debajo del dos por ciento del pib quedando en dos mil catorce en el año pasado en el uno coma noventa y tres por ciento por eso estamos cada vez más lejos de los países punteros

que sea deseable es que necesitamos competir con ellos y que estamos cada vez más lejos porque no dedicamos los medios suficientes estamos lejos de alemania

pero mucho más de las regiones más avanzadas de europa donde la diferencia es enorme por otra parte

de que esta legislatura es la primera vez que las empresas las propias empresas reducen su inversión

unido a otros relacionados con la crisis nos lleva decía él

al modelo económico en el que queremos basar nuestro futuro económico y de desarrollo

y con este panorama el gobierno vasco ha aprobado

un plan con el que habría que hacer un gran esfuerzo primero

y luego para avanzar también a esto se refería el presidente de confebask decía abogar por una economía de alto valor añadido y como base de la misma

innovadora y competitiva capaz de empujar nuestro crecimiento progreso y empleo exige redoblar el esfuerzo en muchos ámbitos pero muy especialmente

por eso digo que cabría esperar que en el nuevo plan de ciencia tecnología e innovación el gobierno comprometiera la financiación necesaria para lograr eso

por hacer algunos apuntes que ilustran esto le diré un elemento fundamental de cualquier plan

el indicador de gasto sobre el pib en general los indicadores económicos de objetivo económico

no está en este plan ha desaparecido es la primera vez

que es además un referente habitual para medir la intensidad del esfuerzo previsto y para contrastar luego

ha desaparecido esto es verdad que permite al gobierno evitar visualizar que el objetivo de este gobierno para dos mil veinte

cuando el objetivo europeo es el tres por ciento es decir nosotros como objetivo para el dos mil veinte nos estamos poniendo

nosotros el gobierno que es quien ha aprobado el plan está poniendo el objetivo para el dos mil veinte

del objetivo medio europeo estamos renunciando a competir en el punto de salida no es que estemos

poniendo como razonable llegar a la media europea es que nos alejamos como objetivo

en realidad deberíamos ir aumentando los fondos para cumplir ese tres por ciento lo que supondría que en dos mil veinte habría que disponer entre la financiación pública y privada que compone

de lo que se prevé que vamos a tener eso solo para llegar a la media europea y nosotros nos quedamos muy lejos de ese compromiso cómo vamos

internacionalmente con nuestros productos necesitamos un desarrollo tecnológico fuerte y mucha innovación para competir internacionalmente y este plan

y cuya esencia se reclama constantemente como

y resulta que se hace como objetivo real que está oculto quedar muy por debajo

que volver a la situación de antes de la crisis supone que nuestras empresas sean competitivas

entre lo que dice el gobierno y lo que pone sobre la mesa para hacer posible eso que dice que es importante

la cuestión es que no es que seamos peores que investiguemos peor hablo de esa diferencia con regiones avanzadas o con la media europea somos igual de eficientes en términos generales el problema es que regiones igual de eficientes en el uso de los fondos nos doblan algo más en la inversión respecto al pib

o no lo es porque puede poner las excusas que quiera pero la realidad es que invierte menos en esta cuestión en realidad ustedes no consideran

fían fundamentalmente la financiación del pcti a dos aspectos por un lado establecen que la aportación de las empresas del sector privado debe ser mayor de aquí al dos mil veinte y por otro dicen que llegará más dinero de europa la financiación se sustenta fundamentalmente en esos dos pilares

pero cómo van a aportar más dinero las empresas eso no se sabe

argumentar que eso permitirá un recorrido al alza y eso ayudará que las empresas inviertan más pero fíjese

decían antes de ayer que la economía real aquella que protagonizan familias y empresas sobre todo las pequeñas y medianas

mejoría de las expectativas empresariales a corto y medio plazo porque lo que es seguro es que la deuda de las empresas no va a desaparecer sola

las empresas deberán sanear los balances y que la inversión tardará en llegar esto pasa especialmente con las pymes el veintiséis por ciento de nuestro tejido empresarial y como

inversión cómo van a aumentar las empresas la inversión si se están saneando aunque haya un crecimiento leve económico hay algo que no encaja en este balance en estos cálculos sobre todo si consideramos que el dinero de las convocatorias del gobierno vasco

es pública en realidad viene de los fondos del gobierno las empresas con la subvención y lo que ellas ponen contratan un proyecto centro tecnológico a otra gente no es solo su dinero el que ponen así

para la inversión privada que también anuncian y en cuanto

a fondos europeos pero resulta que hasta ahora hemos captado fondos europeos

y los propios agentes dicen que estamos al límite que es muy difícil atraer más

eso es difícil no tiene más capacidad las empresas que lo están haciendo hasta ahora y las pymes

en general cómo vamos a ser capaces de aumentar entonces el flujo de fondos europeos

en definitiva es materialmente imposible cumplir el escenario

probablemente vamos a mantener un debate muy similar al que hemos mantenido en otras comisiones pero bueno recordando

mío como consejera es consolidar euskadi como un país

evidentemente a este propósito hemos venido trabajando en diferentes líneas

y de manera especialmente intensa en esta legislatura tratando de hacer que ese sistema sea lo mejor posible dicho esto trataré de volver a explicar

de cero porque usted lo conoce bien pero no nos cansaremos de explicar qué hemos hecho y por qué lo hemos hecho

entorno exista una red bien organizada bien presente en europa y que atienda las necesidades de nuestras empresas porque ese es el objetivo principal

una mayor solidez un mayor valor añadido en los productos está realizando en este momento y que sea más competitivo nos hemos dotado para ello decía de una red vasca de ciencia tecnología e innovación reconocida pero a la vez que reconocida y rica es también compleja en este contexto dado que como país siempre hemos sido autoexigentes

cuando llegamos al gobierno nos detuvimos en analizar un informe que había sido encargado por el anterior gobierno que se había realizado y se había entregado a finales del año dos mil doce un experto europeo que trabaja para la comisión como usted sin duda conoce el señor kevin morgan de una universidad británica que además de conocer bien la arquitectura del sistema su valía potencial y la trayectoria que ha llevado acabo durante estos años

como importante un aspecto de mejora porque evidentemente estos informes se encargan no solamente para analizar cómo está la situación sino para observar puntos de posibles mejoras

pero que la eficiencia y la eficacia de nuestro sistema podía y debía ser mejorado y en eso nos hemos puesto hemos puesto manos a la obra para perfeccionar que como usted bien sabe ha sido bien atendido durante los últimos años por agentes públicos y privados que no me olvido de ellos porque también han hecho un esfuerzo muy importante

pero también un poco de valentía tanto política por nuestra parte pero también valentía por parte de los agentes que emprendían ese cambio qué es lo que hemos hecho y seguimos haciendo todavía en primer lugar establecer

de nuestra estrategia de especialización inteligente la denominada ris tres y aprobar además un nuevo plan de ciencia tecnología e innovación hasta el año dos mil veinte por cierto

todos los agentes son tres diputaciones forales además del gobierno como usted bien sabe las tres universidades que tenemos en este país y además agentes

las dos plataformas pero además agentes empresariales y para ello acordamos de acuerdo con una previsión realista en este final del año dos mil catorce que hasta el año dos mil veinte se iban a invertir entre todos once mil millónes de euros

usted bien sabe el anterior plan de ciencia tecnología e innovación que también se aprobó por unanimidad como lo han sido todos por otra parte preveía una serie de inversiones que dada la situación de crisis fueron imposibles de realizar por tanto y también lo hemos comentado en más de una ocasión y usted lo ha reiterado aquí es cierto que

mejora como se prevé que está mejorando otra cosa es que en ese momento diciembre de dos mil catorce cuando se aprueba este plan la previsión realista nos lleva a ser prudentes y a decir que esos son los millónes que vamos a poder invertir como usted decía públicos y privados y lo que pretendemos es que eso que en determinados momentos y usted también bien lo ha citado se considere privado aquello que en una parte es un fondo público realmente los privados también hagan ese esfuerzo importante y sabemos

que tienen que modificar sus actuaciones pero así también lo dice la unión europea y quizá esos agentes que están invirtiendo mucho más en otros lugares con los que nos estamos comparando hagan eso de una forma diferente a lo que hacemos nosotros pero bueno a partir de aquí lo que queremos es concentrar la actividad de nuestra red vasca de ciencia tecnología e innovación

centrando recursos allí donde disponemos de más capacidades y tratando de diversificar los productos y servicios allá donde más conocimiento tenemos en segundo lugar

reordenar adaptar o como se quiera utilizar la palabra con la implicación de todos los agentes la red vasca de ciencia tecnología e innovación para qué para adaptarla mejor y responder a los nuevos retos socioeconómicos de euskadi pero también para focalizar esos esfuerzos

bien entendida y bien entendible y comparable con el resto de las europeas porque todas las redes europeas todo el sistema de innovación no se mide solamente

dos años de trabajo intenso pero que han dado lugar a que en breve aprobemos el decreto que regulará el nuevo funcionamiento de todo el sistema en tercer lugar hemos revisado y mejorado los programas de financiación enfocados precisamente a la mejora de la eficiencia que era otro de los aspectos que en ese informe se citaban

focalizar la actividad de nuestros agentes si no somos capaces de instrumentarlos adecuadamente en cuanto a sus apoyos en lo que se refiere a convocatorias públicas por este motivo ya las nuevas convocatorias de dos mil quince para los programas etorgai y gaitek

y reforzar la capacidad para desarrollar investigación colaborativa porque si estamos diciendo que necesitamos ganar competitividad también todas esas

hacen referencia a que el tamaño la dimensión para poder competir es importante

ayude a competir y por último hemos establecido un sistema integrado de monitorización y seguimiento del impacto de los programas hasta ahora se había hecho y yo creo que adecuadamente además el seguimiento en el momento de la presentación y en el seguimiento de los objetivos ahora además vamos a medir o estamos midiendo el impacto de esos programas una vez finalizado y a los dos años qué impacto han tenido en desarrollo de empleo en nuevos programas en nuevos productos en nuevos recursos para la empresa qué impacto han tenido esos programas porque desde luego lo que no se mide

y hemos diseñado un sistema desde luego que lo que va a analizar es dónde estamos invirtiendo cómo lo estamos haciendo qué impacto estamos consiguiendo para poder

el origen de esta medición se encuentra en los criterios que se establecen en las propias convocatorias que hemos puesto y desde luego

mejorar la red mejorar nuestros programas y medir el impacto entendemos que es algo relevante que va a acompañar a todos los recursos que tenemos que poner en marcha entre todos me refiero por tanto al esfuerzo que realiza este gobierno en posicionar

no solo el gobierno vasco todas las instituciones públicas y también las privadas estamos incorporando nuevos niveles de exigencia es cierto para eso desde luego tenemos nuestros instrumentos mucho mejor adaptados y mejor preparados y en lo que se refiere a los programas de tecnología

se han incrementado un siete por ciento todas las convocatorias

con criterios orientados a resultados a lo que requiere la empresa a lo que nos está demandando y desde luego es importante

estimule y catalice la inversión privada pero que esa inversión privada sea de verdad inversión privada e implicación de nuestras empresas y sabemos de las dificultades pero todos las sufrimos los públicos y los privados y este compromiso es conjunto y así se ha realizado

sabemos que revisar todo nuestro sistema requiere una gran modificación de nuestro modo de comportamiento pero como

si quieres resultados distintos no hagas lo mismo eskerrik asko

efectivamente consejera si quiere resultados distintos no hagas lo mismo es decir aumente la financiación

porque lleva toda la legislatura hablando de planes de papel sin fondos

hay que trabajar con más eficacia de acuerdo pero eso es una mejora del funcionamiento pero sin dinero sin más dinero no hay impulso

y yo venía aquí mi pregunta estaba dirigida directamente a la financiación

con la reordenación con planes que por cierto tampoco como usted dice y ahora lo comentaré pero

que diga que va a aumentar la financiación que no se remita a la que está en el pcti actualmente que por lo menos tenga la ambición como gobierno de llegar a la media europea del tres por ciento y no parta

que pretenda usted volver a como acabo la anterior legislatura estando por encima de la media europea en inversión

todos y es verdad deseamos lo mismo yo creo que es verdad pero que estamos haciendo lo mismo durante las últimas décadas no es verdad esta legislatura no se ha roto la progresión ascendente y es descendente y eso son los datos del eustat en realidad las empresas

importante es cierto pero no es ese el único problema que tienen

ya le sigo diciendo que las grandes y las pequeñas las pequeñas sobre todo

de actividad al cien por ciento de restructuración incluso y eso imposibilita una apuesta fuerte por la inversión por eso el gobierno tenía que tener como ambición como impulso en un plan que acaba de hacer el poner fondos para

en cualquier caso respecto a la eficiencia que usted ha dicho las convocatorias que eso sí lo está gobernando usted por ejemplo

resulta que no solo ha disminuido en cuantía esta legislatura y que son aún muy inferiores

también en época de crisis es que como hemos comentado alguna vez se resuelven tarde y eso es gestión de este gobierno se resuelven tarde vencido el año

los proyectos que amparan perdiendo el efecto incentivador

europea y hay un caso concreto que también repito porque me parece que refleja muy bien la situación de la eficacia de este gobierno y son las unidades empresariales el caso de estas unidades es más dramático por la supresión de los programas saiotek y de la nueva reglamentación del programa gaitek que los excluye

a la financiación pública que una empresa convencional ya que estas últimas pueden acceder

dotación de personal investigación

y en el programa horizon dos mil veinte y todo esto ha producido un malestar cada vez más manifiesto ustedes dijeron al país que nadie se había quejado y sin embargo es notorio el malestar hasta el punto de que incluso

es decir hay un malestar una preocupación enorme y sigo sin entender por qué excluye usted a estas unidades de la intervención directa y obliga en el mejor de los casos

de producto cuando en realidad su misión va más allá del desarrollo tecnológico último que es prever para las empresas de las que dependen con las que están relacionadas

a medio plazo que no se pueden hacer por la vía de la subcontratación

con investigación tecnológica básica que se acogían a saiotek y ahora están perdidos

cada vez están más preocupados y yo me atrevería a decir más descontentos

usted me hablaba de papeles y planes señor reyes y es cierto que los papeles como usted les llama y los planes requieren

financieros evidentemente pero no me negará que con recursos y sin estrategia tampoco se llega a ningún sitio por tanto las dos cosas son importantes en este caso y le tengo que decir concretamente

en euskadi hemos aumentado del uno coma ochenta y uno al uno coma noventa y nueve y es cierto que el año dos mil trece fue un año dramático para todos para las instituciones públicas y para las privadas y es cierto que se

tal como estaban previstos en presupuestos por tanto las dificultades son las dificultades y las sufrimos todos pero decía los indicadores financieros son importantes de presupuestos pero cuando medimos la eficacia la calidad de un sistema de innovación

de los veinticinco medidores que hay de los veinticinco objetivos que se plantean uno

y hay otros importantes en los que seguimos bien posicionados y le voy a hablar de algunos de ellos

prácticamente y los salarios aumentaron en un cero coma quince por ciento luego hemos mantenido salarios y personas se mantienen los activos principales de conocimiento

y en particular en la administración pública pasamos

respecto a la adicionalidad fuimos en el camino correcto la financiación privada de las empresas supuso el cincuenta y siete por ciento

de doscientos diez en el dos mil doce a doscientos diecisiete en el dos mil trece en el peor momento

los agentes de la red vasca de ciencia tecnología e innovación captaron cincuenta y siete millónes de europa una adicionalidad importante respecto a dos mil doce doce millónes más

en dos mil catorce euskadi se mantuvo entre las regiones europeas de alta innovación y por primera vez euskadi se equipara con el grupo de países europeos de alta innovación porque insisto los recursos son importantes pero los indicadores son veinticinco y los recursos financieros son uno de hogeita bost se demuestra que la red sigue siendo y que el país sigue siendo altamente innovador

de los recursos que han ido menguando en cuanto a administración pública que es lo que mide eustat pero vamos a medirlos todos

es cierto de esos treinta y cuatro millónes de bajada veintitrés eran del estado

es esa pero no contentoscon eso en dos mil diez eran ciento treinta y uno millónes y en dos mil trece acabaron siendo únicamente treinta y cuatro hirurogeita bi en bi mila hamabi más allá dos mil catorce

y llegamos de ciento noventa y cuatro coma cuatro millónes en dos mil trece a doscientos dos

en los programas de tecnología como bien le decía de los ciento veinticuatro millónes de dos mil doce hemos pasado a ciento treinta y tres millónes

diferentes los programas son diferentes y probablemente no hemos sido capaces de explicarlos en su conjunto es posible que no los hayamos explicado bien pero insisto que van en la línea correcta y además hemos incorporado una nueva herramienta de acuerdo a la normativa europea

una línea de financiación que no existía hasta este momento en euskadi tanto para pymes y midcaps pero también para centros tecnológicos para inversión cosa que no existía hasta este momento un fondo hasta cien millónes de euros hemos constituido además dos centros de fabricación avanzada por un valor de trece coma cinco millónes de euros

y como ve vuelvo a la estrategia que sigue siendo importante y para europa seguimos siendo importantes

desde luego más pronto que tarde también en esta cámara además de a la financiación que sigue siendo importante y confío en que podamos irla subiendo veamos otras cosas que los demás
son capaces de ver en nosotros eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

por tanto todos estos comercios estarían abiertos en toda euskadi si no hubiéramos puesto ese recurso

pero no solamente se interpuso el recurso sino que además se sigue aplicando la ley de actividad comercial de euskadi como consecuencia de ese recurso y como consecuencia de una ley aprobada en este parlamento gracias a eso los comerciantes vascos aquellos que tienen más de ciento cincuenta metros cuadrados mantienen únicamente la posibilidad de abrir ocho días

setenta y dos horas semanales y dos periodos de venta promocionales son fruto de un acuerdo y de una ley establecida donde además fue respaldada por el conjunto del consejo consultivo de comercio por tanto lo que hacemos

de hacer cumplir esa ley de la que nos hemos dotado en esta cámara porque igual de condenable es aplicar políticas de apertura desenfrenada que llevan a un callejón sin salida contra las que estamos desde luego como gobierno y hemos hecho todo lo que había que hacer pero igual de denunciable

que algunos quieren imponer a toda costa para que se habrá un día festivo

vamos a estar en los dos ámbitos y vamos a seguir estando desde este gobierno y desde todas las instituciones

una situación que hace que algunos no puedan verse afectados por esa ley de la que nos hemos dotado en esta cámara eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea casanova jauna zurea da hitza

señora tapia quizás le he dado pie yo a que se desvíe del tema porque

la actitud del gobierno municipal de bilbao de presionar a los comerciantes en la ciudad de bilbao hablaremos sobre esas cuestiones que usted me ha planteado y sobre la actitud del gobierno vasco

que a pesar de que ustedes dicen que cuentan con una interlocución permanente con todo el sector tampoco les interesa mucho traer esa ley aquí antes de las elecciones o activar las comparecencias antes de las elecciones porque saben que en realidad tienen a todo el sector y a toda la sociedad en contra de cualquier paso

voy a hablar de bilbao por ejemplo donde el alcalde el alcalde anterior ya desafortunadamente fallecido el señor azkuna decía cosas como

ocho festividades al año al menos los chinos han empezado a abrir como champiñones si los nuestros no abren peor para ellos los chinos comen duermen y procrean en sus tiendas no sé dónde mueren

o abrimos o espabilamos o cada vez tenemos más chinos el señor areso los comercios desaprovechan la oportunidad del mundial de baloncesto de abrir el domingo y ahora señor aburto el comercio bilbaíno

y además de esas declaraciones hay una serie de medidas como el intento felizmente frustrado entre otras cosas por la intervención de euskal herria bildu de recalificar la plaza circular para

el cambio de plan general de ordenación urbana para favorecer la apertura de centros comerciales en el centro

de señalar a los comerciantes como los malos de la película euskal dendak dice que bilbao regula el comercio a la medida de la gran vía

porque además lo que se haga en bilbo efectivamente no tiene solo influencia en bilbo tiene influencia en bilbo y tiene influencia en toda bizkaia

no van a padecer las consecuencias de una apertura en festivos generalizada en bilbao los comerciantes usted sabe muy bien y efectivamente así es tienen ya el derecho a abrir

no lo hacen porque les guste perder dinero entre otras muchas consideraciones por tanto no tienen ningún sentido

de sabotear o de no permitir un proyecto a una ciudad abierta y turistificada por no abrir los domingos que dejen en paz a los comerciantes que ellos saben muy bien lo que tienen que hacer y que no se promueva

eskerrik asko presidente andrea señor casanova vuelve a mezclarlo todo apertura generalizada dónde se está cumpliendo una ley se está tratando de hacer cumplir una ley

ocho festivos al año cuando ellos decidan y si así lo deciden nada más y no me diga que no hay comercios que abren desde luego no lo sé en bilbao

pero todos los comercios de la parte vieja que tienen menos de ciento cincuenta metros cuadrados están permanentemente abiertos porque la ley les ampara por qué no en bilbao que ellos decidan evidentemente pero no decida usted por ellos aquellos que quieran abrir y se

ellos que puedan abrir de acuerdo con lo que ellos decidan y desde luego el gobierno vasco ha el tema de los horarios comerciales en zonas de gran afluencia turística a solicitud de los dos municipios bilbao y donosti y de acuerdo con lo que ellos nos han solicitado con lo acordado en el pleno en cada uno de los dos municipios nada más y por supuesto la ley

está en este parlamento está ya aquí no se ha retrasado con el acuerdo de todos los que estaban preparándola aquí está y de acuerdo sobre todo insisto

con el acuerdo plenario de los dos municipios eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

buenos días señora consejera señor consejero señorías señora consejera el programa lehiatu arrantza previsto en el decreto

del dos mil diez regula las ayudas a la transformación y comercialización de los productos derivados de la pesca y la acuicultura

fueron por un lado la necesidad de adaptarse a la reforma de la normativa comunitaria

la de acometer los cambios necesarios para adaptarse a las nuevas realidades de la transformación y comercialización en este sector de actividad se apuesta por priorizar la generación de valor añadido en el sector de transformación

potenciar la dinámica socioeconómica en las áreas geográficas afectadas y así como fortalecer

concretamente las ayudas están encaminadas a la consecución de los siguientes objetivos la mejora de las condiciones de trabajo

de salud pública o la calidad de los productos la obtención de productos de alta calidad para mercados altamente especializados

una mejora utilización de especies poco aprovechadas subproductos residuos

la aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo de métodos innovadores de producción la comercialización de productos procedentes esencialmente

es decir un programa de ayudas vital para nuestra industria agroalimentaria señora consejera

a la hora de solicitar ayudas no se pueden solicitar estas para hacer obras con fecha anterior a la fecha de la orden de subvención sin embargo

y necesitan seguir adaptándose a las necesidades

qué va a hacer su gobierno con este tema es por ello porque es importante para el sector y el sector es de vital importancia para nosotros que nos gustaría saber para cuándo prevé que publiquen la orden subvencional

referida a este año en curso y por extensión ya que el decreto ha decaído por su vigencia para cuándo va a salir también un decreto nuevo

eskerrik asko presidenta andrea como usted bien decía

previsto en el decreto doscientos veintiséis barra dos mil diez sobre ayudas a la transformación y comercialización de productos derivados de la pesca y acuicultura se desarrolló dentro del marco normativo comunitario de referencia en ese momento en materia de ayudas a productos pesqueros y acuícolas mil ciento noventa y ocho barra dos mil seis del consejo de veintisiete de julio del dos mil seis relativo al fondo europeo de pesca

el desarrollo sostenible de la política pesquera común en vigor hasta dos mil catorce por ello el citado decreto ha finalizado su periodo de vigencia y en consecuencia los fondos que se estaban utilizando también para el periodo dos mil catorce dos mil veinte el marco comunitario de referencia en materia de ayudas a los productos

del parlamento europeo y del consejo del quince de mayo del dos mil catorce relativo a lo que ahora se denomina

que ha surgido como instrumento financiero para poner en marcha y alcanzar los objetivos establecidos en la política pesquera común

este departamento se encuentra en estos momentos de acuerdo con esa nueva normativa desarrollando la normativa correspondiente en euskadi para contribuir a la consecución de los objetivos de esta política pesquera común

respecto a las ayudas de transformación y comercialización de productos de los que me hacía referencia el nuevo fondo el nuevo programa lehiatu arrantza está previsto

en una convocatoria que tendrá una dotación de un millón novecientos cincuenta y uno mil euros aproximadamente

que la normativa esté desarrollada y con el visto bueno de la unión europea porque se ajusta a lo que es el nuevo decreto sabemos

a las previsiones de nuestras empresas pero lo que primamos en este caso es la seguridad jurídica sobre cualquier otra cosa eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea fresno andrea zurea da hitza

es cierto que el veinticinco de enero el parlamento europeo y el consejo llegaron a un acuerdo político

acuerdo esencial para que el fondo pudiera entrar en vigor señora consejera

nosotros y nuestra preocupación es que mientras las personas que realmente están haciendo o quieren hacer inversiones y no se pueden acoger a este plan no sería necesario no sería hacer unas medidas arbitrarias para agilizar las ayudas

en la realidad de la política pesquera común debidas a que puedan ser aprobadas adelantándose eso sí con participación a la inspección funcionarial

se encuentren dentro de la subvención de la política pesquera común y como realmente es así y

de bruselas que está acordado estamos de acuerdo pero mientras tanto

se quedan ahí paralizadas no se les puede ayudar sailburua tapia andrea zurea da hitza

lo primero que tenemos que hacer es garantizar seguridad jurídica para aquellos que van a ser destinatarios de las ayudas

que no haya sido previamente acordado con la unión europea porque puede ser susceptible de necesidad de devolución de esas ayudas eso sería casi peor que llevar un decreto una orden en tiempo un poco más retardado nos está ocurriendo exactamente lo mismo con los nuevos programas de investigación

tienen nueva normativa nuevo periodo de programación como usted lo quiera denominar y nos tenemos que atener a todas y cada una de las normativas de la unión europea y si no tenemos el visto bueno

a activarlas puesto que serían recurribles de facto y entendemos que eso insisto sería muchísimo peor que llevarlas tarde seguridad jurídica ante todo aunque sabemos que para las empresas puede resultar problemático el que la orden salga un poco más tarde pero no podemos arbitrar nada que no tenga el visto bueno de la unión europea sabemos por experiencia que eso puede ser realmente un aspecto problemático en el desarrollo de sus actividades a futuro esa es la situación pero estamos acelerando al máximo toda la tramitación

por tanto a lo largo del mes de septiembre esa orden de ayudas estará en marcha eskerrik asko

zurea da hitza gracias presidenta señor consejero

al paro y la pobreza que en opinión de upyd son los

padece la sociedad vasca y especialmente una parte importante de esa sociedad vasca en dichas sesiones del pleno monográfico se aprobaron cincuenta y cinco resoluciones todas ellas de gran importancia para mejorar la vida

de entre estas cincuenta y cinco propuestas de resolución que se aprobaron en aquel pleno destacamos algunas de ellas y en concreto al debate de hoy hemos querido traer

veintiuno ya que son propuestas de resolución que establecen un plazo que ya ha vencido y por lo tanto preguntamos al consejero si efectivamente estas propuestas de resolución fueron tomadas en consideración por parte del gobierno y si han sido cumplidas

el parlamento vasco con la intención de reducir al máximo las tasas de precariedad en el trabajo y las irregularidades en las contrataciones insta al gobierno vasco a que elabore

de trabajo con recursos humanos y materiales suficientes orientados a la lucha contra el empleo sumergido

de la legalidad le pregunto si está hecho este plan específico la propuesta de resolución número nueve decía lo siguiente se pedía al gobierno que diseñe

y ambiciosa para reforzar la inclusión laboral de los jóvenes le pregunto si se han diseñado y se han remitido a la cámara esas bases que

y la propuesta de resolución número veintiuno con la que este parlamento instaba al gobierno a remitir al parlamento antes de finalizar el primer trimestre de este año el nuevo plan y estrategia para la inclusión social activa

de protección social también le pregunto si este plan y esta estrategia han sido remitidos a este parlamento consideramos que todas estas propuestas de resolución son de gran importancia ya que afectan directamente a cuestiones de gran calado como el empleo el empleo juvenil y la inclusión por todo ello le interpelamos señor consejero para que explique en qué estado de desarrollo se desarrollo se encuentran estos planes y estas estrategias

recogidas en las resoluciones del pleno monográfico de noviembre han comenzado a implementarse en qué nivel de desarrollo se encuentran y qué acciones llevará a cabo

en el corto plazo fue un pleno monográfico de extraordinaria importancia en aquel pleno monográfico los distintos grupos presentaron iniciativas

se plantearon argumentos de peso y se instó al gobierno a tomar una serie de decisiones yo considero que la mayor parte de esas propuestas de resolución que salieron aprobadas han sido incumplidas por parte de este gobierno pero en todo caso yo me refiero a esas concretas cuyo plazo ha vencido

de resolución la importante también es analizar qué es lo que el gobierno vasco ha hecho durante todo este tiempo en concreto durante toda la legislatura

a la crisis económica para crear empleo estable y de calidad qué es lo que ha hecho este gobierno

a la pobreza también para hacer frente a la pobreza energética

ciertamente lamentable muy preocupante y por lo tanto esto

hay datos que ciertamente son negativos y desde luego no creo que este gobierno pueda sentirse orgulloso en relación

qué hemos hecho para hacer frente a la crisis pues yo creo que estos plenos

y todas las acciones del gobierno pues en muchísimas de las acciones hemos hecho precisamente eso política para hacer frente a la crisis y hemos desarrollado

en aquel pleno y hemos desarrollado las acciones en algunos casos no lo hemos remitido formalmente a la cámara

esa pregunta en relación a la resolución número ocho la lucha contra la precariedad y la explotación laboral en todos los ámbitos donde se producen son objetivo prioritario de este gobierno y estoy seguro que lo serían de todos los gobiernos conformados con todos los grupos parlamentarios presentes en esta cámara para lograr ese objetivo contamos con la inspección de trabajo fundamentalmente

la lucha contra el empleo irregular y asegurar el empleo de calidad que señala la normativa las actuaciones de la inspección se desarrollan mediante la ejecución de campañas planificadas bien a petición de diferentes organismos y en última instancia también como respuesta a las denuncias que los trabajadores y trabajadoras

puedan presentar sobre presuntas irregularidades detectadas en cualquier ámbito laboral disponemos de una plantilla de funcionarios y funcionarias

lo que nos condiciona a la hora de tomar decisiones en esta materia y por lo tanto a la hora de desarrollar todo lo que quisiéramos no obstante en nuestro deseo de mejorar el trabajo de esa inspección atendiendo a la demanda del parlamento hemos hecho un refuerzo efectivo en la inspección de trabajo del país vasco

tres inspectoras para reforzar las inspecciones territoriales y estamos pendientes actualmente de la convocatoria del concurso de traslados a nivel estatal que no depende de nosotros que permitirá cubrir el resto de vacantes existentes que repito no dependen de nosotros y por otro lado en el contexto de dificultad para el aumento de plantillas en la administración que tengo que reconocer y ustedes conocen también

hemos iniciado un proyecto que supone el aumento de otras seis nuevas plazas de inspectores de trabajo y seguridad social

mejor vertebración de la estructura que tenemos para contar con un mayor número de efectivos y desarrollar las funciones de control y vigilancia de las relaciones laborales

en relación a la resolución número nueve que usted ha citado señor maneiro

de empleo y políticas sociales el plan de acción dos mil quince dentro del plan de empleo dos mil cuatro dos mil dieciséis allí ciertamente dimos la explicación que hoy reitero mas resumida

cabía destacar el de favorecer el empleo y la inserción laboral de las personas más desfavorecidas y especialmente de la juventud

así entre los programas operativos que conforman el plan se establece uno específico de fomento del empleo joven está dotado con más de treinta y cuatro millónes de euros para este año y se estructura en cuatro ejes y los ejes se concretan en veintidós iniciativas de los que usted tiene un dossier completo

de seis acciones las ayudas a jóvenes promotores para nuevas ideas empresariales y la puesta en marcha de los negocios y la consolidación de los mismos en segundo lugar el convenio con gaztempresa el tercero el programa urrats bat

el quinto el programa junior cooperativas y el sexto acciones

el segundo de los ejes que es el de la formación dual se desarrolla a través de las siguientes acciones

ambas líneas están en ejecución por eso le digo que sí están en ejecución y son fruto de colaboración entre lanbide y el departamento de educación política lingüística y cultura

no con los resultados que nosotros tratamos de conseguir pero no porque no ponemos empeño en ello contratación de jóvenes en empresas vascas en el exterior

quinto la orientación específica a jóvenes y el cuarto

es el del talento joven y se ejecuta a través de las siguientes acciones también seis las becas de internacionalización el programa

el apoyo al retorno juvenil que está todavía en fase de diseño

las becas del proyecto naciones unidas las becas de especialización en cooperación y desarrollo y las ayudas a personas cooperantes

segundo lugar en relación a la resolución número veintiuno

el año pasado como consecuencia de la evaluación inicial del plan de inclusión activa dos mil doce dos mil dieciséis decidimos abordar una rearticulación del plan y hacer una nueva catalogación de las actuaciones con el fin de ajustarlo a la realidad actual

combatir la pobreza y la exclusión social en principio la evaluación evidencia hay que reconocerlo que estamos lejos de los objetivos propuestos en su origen

creemos ahora lo podemos decir que eran poco realistas en este proceso de evaluación se consultó a todas las instancias implicadas y su resultado

este año dos mil quince el día veintitrés de enero y en relación a la priorización de las líneas de trabajo del plan de inclusión activa

de esta comisión del veintitrés de enero fue en primer lugar rehacer el diagnóstico que hemos dicho que era poco realista en el que se basaba aquel plan

y generales de acuerdo a las prioridades de las administraciones públicas en colaboración con el resto de los agentes sociales

en tercer lugar establece qué actuaciones concretas deben mantenerse en el nuevo plan de inclusión y establecer

deberán introducir en cuarto lugar valorar la posibilidad de establecer por parte de las administraciones públicas

y en quinto lugar la creación de grupos de trabajo de carácter técnico en los que participen representantes de los distintos niveles de las administraciones

y que han participado hasta ahora en la gestión de dicho plan eskerrik asko toña jauna maneiro jauna zurea da hitza

sí gracias señor consejero efectivamente yo le preguntaba

a la crisis económica al desempleo a la precariedad laboral a la desigualdad y sé que ustedes han puesto en marcha una serie de acciones una serie de programas una serie de ejes pero lo cierto es que los resultados

considerarse como satisfactorios en absoluto creo que podemos decir a día de hoy

que este gobierno ha fracasado en lo que se refiere a la lucha contra el desempleo y la lucha contra la precariedad laboral yo creo que esos son los resultados más allá

o acciones o hayan venido anunciando la puesta en marcha de una serie de medidas

y efectivamente yo estuve en esa comisión del lunes y no puedo sentirme en absoluto optimista y no creo que usted pueda sentirse satisfecho de lo que ha realizado

que siguen padeciendo miles de ciudadanos esta es la conclusión a la que nosotros llegamos ya digo dos años y medio después de iniciada legislatura nosotros efectivamente hacíamos referencia a tres propuestas de resolución concretas y creo que no ha sido cumplida ni una sola de ellas más allá de lo que usted ha dicho como conclusión general podemos decir y en algún caso usted lo ha reconocido que ninguna de estas propuestas de resolución ha sido cumplida por parte de este

ante la cual nos encontramos y además había otra serie de propuestas de resolución incluidas entre esas cincuenta y cinco que también consideramos que han sido incumplidas por parte de este gobierno

instábamos al gobierno a comprometerse a perfeccionar y fortalecer el sistema vasco de protección social ante quienes pretenden recortarlo tampoco vemos ahí que ha habido una posición

o cuando pedíamos al gobierno vasco la presentación en el plazo de seis meses de un estudio sobre la pobreza real derivada de la precariedad laboral y la insuficiencia

pero me gustaría también preguntarle cómo va el cumplimiento de ese mandato parlamentario o lo que se refiere a las ayudas de emergencia social cuando se instó

destinada a las ayudas de emergencia social y lo mismo en relación a las ayudas a la conciliación creo que este gobierno está permanentemente los mandatos parlamentarios o un buen número de ellos creo que este gobierno los está incumpliendo y un buen ejemplo son esas propuestas de resolución aprobadas en aquel monográfico muchas de ellas muchas de ellas podemos decir a día de hoy que se han incumplido por lo tanto en nuestra opinión podemos hablar de un fracaso evidente por parte de este gobierno en lo que se refiere a la creación de empleo y en lo que se refiere a la calidad creado en euskadi más allá de planes y programas puestos en marcha los resultados son los que son el paro se mantiene insostenibles la desigualdad se ha incrementado la pobreza se ha incrementado se ha incrementado también el empleo temporal y el empleo precario hay miles de ciudadanos y familias que no pueden llegar a final de mes y no tan jóvenes están padeciendo una serie de salarios absolutamente miserables y miles de jóvenes vascos han optado en los últimos tiempos

determinados factores externos positivos como puede ser la devaluación del euro por parte del banco central europeo o la bajada del precio del petróleo que nos puede

optimistas en relación al futuro de las empresas pero son factores externos si analizamos qué es lo que ha hecho este gobierno la conclusión es que prácticamente no ha hecho nada y en todo caso ya digo que los resultados son ciertamente lamentables el peso de la industria ha bajado un tres por ciento durante la crisis por lo tanto ya digo podemos concluir que el gobierno a día de hoy ha fracasado en lo que se refiere a la creación de empleo y podemos hablar también de inmovilismo del gobierno vasco apenas ustedes han hecho nada salvo incumplir los mandatos parlamentarios hay por lo tanto una ausencia evidente de reformas de calado de decisiones importantes para que cambie

en marcha planes ejes programas pero señor consejero los resultados son los que son los resultados son malos y los ciudadanos

señor maneiro esta segunda intervención suya tiene

con la interpelación nosotros

tenemos de los mejores resultados del estado en esa materia y partimos de niveles más cercanos a los europeos que a los del estado no me voy a sentir nunca satisfecho

nunca porque siempre tenemos que perseguir mejorar lo que hacemos y si incumplimos algunas cuestiones como

a la que este gobierno ha criticado y con la que no está a favor y ese empleo de calidad fundamentalmente o ese empleo indecente no lo genera este gobierno pero bueno yo voy a responder por lo menos a las preguntas que usted me ha hecho en la interpelación en relación a la inspección de trabajo creo que la situación que se ha llevado es incuestionable

supone un refuerzo evidente en lo que podemos hacer luchar contra el empleo sumergido contra las jornadas abusivas contra el incumplimiento de condiciones de trabajo y contra el resto de vulneraciones

pero como he explicado en mi primera intervención nuestra capacidad de actuación está condicionada por estar encuadrados

en el sistema de inspección de trabajo y seguridad social estatal en segundo lugar y con respecto a la inclusión de las personas jóvenes en el mercado laboral las bases la estrategia los recursos las dotaciones presupuestarias están definidas siempre serán insuficientes pero son las que podemos poner en marcha y son ambiciosas con los recursos que este gobierno dispone

esas actuaciones están descritas en el vigente plan de empleo dos mil catorce dos mil dieciséis el lunes comparecimos como he dicho antes para explicar esas acciones en dos mil quince

vale no solo están diseñadas y son conocidas sino que se están aplicando

como nos comprometimos en aquella comisión nos daremos a conocer y por último

son rehacer el diagnóstico en el que se basaba aquel plan reformular los objetivos del plan ver qué actuaciones deben mantenerse y cuáles nuevas hay que adoptar

en definitiva señor maneiro estamos tratando de impulsar un plan realista y ajustado

si la pobreza se incrementa en este país no le cuento la que se está incrementando en el estado no se la cuento porque afortunadamente gracias al sistema de protección social con el que este país se ha dotado que repito siempre será también insuficiente porque siempre se podría hacer más afortunadamente los niveles de desigualdad en nuestro país

no han crecido nuestros sistemas de protección la renta de garantía de ingreso

diversas cuestiones pero ciertamente búsquelas usted en el resto de comunidades autónomas

en el estado español y no las va a encontrar y si las encuentra será ciertamente con unas dotaciones presupuestarias que suponen todas ellas en su conjunto menos

dicho al revés más del cincuenta por ciento de todas las dotaciones de protección social que se hacen en el estado provienen de la comunidad autónoma vasca de nuestro país

podremos hacer más pero hacemos lo que podemos lo que no podemos es imposible eskerrik asko eskerrik asko toña jauna

señor consejero usted ya sabe qué pregunta le voy a trasladar

que en sestao y en lasarte producen las declaraciones del director

hablando de un eventual cierre de los centros formativos que lanbide tiene en estas dos localidades esta es una cuestión muy importante para nosotros y sin más preámbulos le formulo